lehendakari es evidente que el señor lezertua va a ser elegido ararteko con el voto favorable del partido nacionalista vasco el partido socialista de euskadi y el partido popular para nosotros es el único candidato y es el que va a salir elegido no tenemos dudas por lo tanto sobre la cuestión

le deseamos suerte en su nueva función y esperamos que sea capaz

a los retos que tiene por delante desde el punto de vista de su currículum trayectoria

capacidades o actitudes no tenemos dudas de que está preparado en principio para ejercer su cargo y sus responsabilidades efectivamente

o al menos no parece que no lo esté nosotros vamos a votar en blanco fundamentalmente por tres razones la primera de las razones

por el partido nacionalista vasco el partido socialista de euskadi y el partido popular para elegir y no presentar a su candidato mesedez isiltasuna
cómo se han hecho las cosas el pasado día veintitrés de diciembre leíamos en un medio comunicación que el partido nacionalista vasco proponía al jurista

ararteko el pasado día veinte de febrero leíamos en un medio de comunicación que el partido nacionalista vasco el partido socialista de euskadi y el partido popular

a manu lezertua y a adelgazar la institución y finalmente el pasado día diecisiete de mayo leíamos que el señor lezertua será nombrado ararteko las elecciones celebradas el pasado domingo a mí me parece razonable

quien proponga un nombre para ejercer el cargo del ararteko es lo más razonable

al partido socialista de euskadi y al partido popular y que sean ellos quienes lleguen a un acuerdo y lo pacten es también razonable me parece comprensible

hecho público y públicamente se tenían que haber dado las razones de la elección de ese nombre se tenían que haber explicado las razones por las cuales se había elegido a esa persona como nuevo ararteko además estos partidos en nuestra opinión

del señor lezertua para que este explicara en esa comisión su experiencia su currículum su bagaje sus capacidades y su programa y sus prioridades sin embargo no lo hicieron fue quien tuvo que pedir la comparecencia del señor lezertua para que en esa comisión el señor lezertua pudiera explicar las razones por las cuales se siente capacitado para

los partidos políticos que lo eligieron decidieron no pedir la comparecencia de esta persona

de cara al futuro habría que corregir en aras a la transparencia

pueda saber qué persona va a ser elegida ararteko y para que los grupos parlamentarios también tengamos la capacidad y la posibilidad de preguntarle por las razones por las cuales se siente capacitado para ejercer esa labor

en dicha comisión le hicimos varias preguntas y aunque es cierto que parece una persona preparada no fue lo suficientemente convincente con la necesidad de redimensionar la institución reducir personal y salarios y elegir de otro modo a los trabajadores aunque sea algo que nos corresponde a nosotros como parlamentarios

que él esté de acuerdo y no lo vimos lo suficientemente comprometido en esos objetivos y tercera razón tampoco fue excesivamente conciso

a día de hoy la sociedad vasca se enfrenta a retos de extraordinaria importancia relacionados con el mantenimiento del estado del bienestar con el derecho a una vivienda digna

una serie de retos que ya el ararteko anterior le puso encima de la mesa y explicó al conjunto de la sociedad cuáles exactamente eran en fin es obvio que somos nosotros los máximos responsables de solucionar los problemas de la gente

a los retos de la sociedad pero el señor lezertua no se comprometió a demasiadas cosas es por esto por lo que nosotros finalmente decidimos abstenernos en todo caso es el candidato elegido por el partido nacionalista vasco

y evidentemente nosotros le deseamos suerte eskerrik asko maneiro jauna

señor lezertua no nos parece tan importante en esta ocasión quién

de las características sino la idoneidad de la persona propuesta

que la propuesta era la del señor lezertua para ocupar este importante cargo este importante puesto para el que hoy sometemos a votación

a la hora de aprobarlo y acordar su nombre nos parece una persona con un acreditado perfil con un acreditado recorrido y con

para el importante reto que tiene que afrontar y en ese sentido por eso la bienvenida y por eso nuestro acuerdo

entre ellos fundamentalmente dos fundamentalmente dos adecuar y seguir adecuando la institución del ararteko

ciudadanas y para eso deberá de tener también el apoyo

para prestar un servicio al ciudadano también adecuado a las nuevas exigencias

es el de adecuar la oficina a un compromiso también manifestado por el propio candidato por el propio señor lezertua por el propio ararteko

adecuar la oficina a unas nuevas exigencias también presupuestarias y racionalizar vía reducción esa oficina a lo que los ciudadanos reclaman un ararteko una oficina de ararteko más eficaz

como hasta ahora pero adecuando y racionalizando la oficina desde un punto de vista presupuestario ese es el compromiso

esa es la exigencia o una de las exigencias que el partido popular

de manifestar nuestro apoyo a su candidatura y esperamos que así se

adecuado y desde luego a la altura de las nuevas exigencias darán buena cuenta del éxito del señor lezartua en este importante reto muchas gracias

gracias presidenta el grupo socialista votará a favor de la candidatura de manu lezertua como ararteko y creemos antes y después de su comparecencia en la comisión de derechos humanos le doy las gracias

nos explicó cuáles eran sus intenciones respecto al ararteko nos parecía entonces y nos parece ahora que es la persona más adecuada para ponerse al frente de esta defensoría y le avala su formación como letrado del gobierno vasco

dentro del consejo de europa del que ahora es director del congreso de poderes locales y le avala también su experiencia en la defensa de los derechos humanos y los derechos

y le avala también para nosotros su consideración positiva de que la ley de partidos era acorde con la convención de derechos humanos y digo que es una garantía porque al hacer esta valoración el señor lezertua demostró que no se puede ser

de derechos humanos que tenía criterio moral y por eso nos parece absolutamente positivo y por lo tanto creemos que el señor

y para atender a los ciudadanos ante la desatención o irregularidades de la administración o para hacer recomendaciones de mejora de los servicios públicos por lo tanto entiendo que será un digno sucesor de las personas que le han sucedido como arartekos

hasta este momento confiamos en que sea capaz al frente de su equipo de seguir desarrollando la institución

a las nuevas demandas que ahora tiene la ciudadanía la de la crisis económica que está golpeando especialmente a las personas más indefensas y que exige del ararteko una especial sensibilidad y la realidad de un cambio total de paradigma de las relaciones entre la administración y los ciudadanos y en esa tarea contará con el apoyo del grupo socialista de hecho las enmiendas que hemos presentado a la proposición de ley que se va a debatir en esta cámara para actualizar la ley del ararteko van precisamente en la dirección de aumentar la conexión del ararteko con el parlamento y con la sociedad y dotarle

por eso entre otras cuestiones en las enmiendas hemos propuesto la comparecencia preceptiva de los aspirantes a ararteko antes de su elección

y también que a partir de ahora el adjunto o adjunta sea también elegido por el parlamento así mismo establecemos cautelas para que la vacante del ararteko no se prolongue indefinidamente y planteamos que la ley recoja

que la institución deberá contar con los recursos humanos y materiales suficientes para desarrollar sus funciones nada más y muchas gracias

manuel lezertua rodríguez no parecía tarea fácil encontrar una persona

un profesional con una sólida formación jurídica una dilatada carrera profesional al servicio de los ciudadanos desde el servicio público

luego en el tribunal constitucional y posteriormente en diferentes instituciones europeas como el tribunal europeo de derechos humanos y el consejo de europa desarrollando la mayor parte del tiempo actividades estrechamente vinculadas a la defensa y promoción de los derechos y libertades fundamentales de las personas

para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos su programa de trabajo es y debe ser cumplir y hacer cumplir la ley a las diferentes administraciones públicas vascas no como un órgano jurisdiccional sino ejerciendo una magistratura de persuasión en este sentido tanto su formación

y su profundo conocimiento de los diferentes niveles institucionales y administrativos suponen una garantía de éxito en la tarea que a partir de hoy le va a encomendar este parlamento

que supera notablemente la mayoría de tres quintos necesaria para su elección hemos podido escuchar así términos

acuerdo a espaldas de los ciudadanos o pacto secreto sin más objetivo que disimular bien

o bien su indisimulada práctica de métodos impositivos en el ejercicio de la acción política

el diálogo como un contrato de adhesión cuando no como un acto de sumisión del resto a sus posiciones no son los más indicados para dar lecciones de negociación acuerdo y consenso

capaz de concitar un amplísimo consenso cincuenta y tres parlamentarios de setenta y cinco

otros lanzan un señuelo propio con marca de la casa y sin otro objetivo que marcar territorio independencia política

persuasión defensa radical de los derechos humanos reconocimiento y defensa de la diversidad como valor social incardinación en el marco europeo y mejora continua son algunos de los valores con los que se ha comprometido manuel lezertua en el ejercicio del cargo de ararteko confiamos en sus compromisos

los mayores éxitos en ese empeño siempre en beneficio de las personas eskerrik asko eskerrik asko iturrate jauna jarraian

reyes martín vicente rojo solana natalia

semper pascual francisco de borja

arieta araunabeña ibarzabal juan antonio arraiz barbadillo hasier

jone blanco de angulo eva

carro iglesias javier casanova alonso iker

manuel lezertua manuel lezertua manuel lezertua luix barinagarrementeria manuel lezertua manu lezertua manuel lezertua

manuel lezertua manuel lezertua manuel lezertua manu lezertua

luix barinagarrementeria manuel lezertua manuel lezertua

manuel lezertua manuel lezertua manuel lezertua manuel lezertua manu lezertua

manuel lezertua manuel lezertua luix barinagarrementeria luix barinagarrementeria luix barinagarrementeria manuel lezertua manuel lezertua manuel lezertua manuel lezertua

manuel lezertua luix barinagarrementeria manuel lezertua manuel lezertua manuel lezertua

manuel lezertua manuel lezertua

manuel lezertua lezertua rodriguez jauna

luix barinagarrementeria manuel lezertua manuel lezertua luix barinagarrementeria manuel lezertua luix barinagarrementeria manuel lezertua manuel lezertua

tinbreak ez du funtzionatzen orduan bozketa proposatzen dizuet eguerdirako uztea no funciona el timbre y por tanto os propongo dejar hasta el mediodía eguerdiko bozketak

baizik eta askotan ez dute errespetatzen decía el señor erkoreka en la respuesta a la interpelación que le formulamos desde el grupo popular

acusación no entrañe denuncia es que las resoluciones judiciales como las resoluciones de este parlamento y las de cualquier otro poder público son susceptibles de crítica

de justicia sí señor erkoreka señor lehendakari que aprovecho para decírselo ahora que está

pero cuando las críticas tienen sistemáticamente el objetivo de presionar y desprestigiar la acción de la justicia pues llama mucho la atención y

resoluciones judiciales decisiones de los tribunales de justicia que no les gustan al partido nacionalista vasco a este gobierno o a los dirigentes del partido nacionalista vasco que apoyan a este gobierno

respeto institucional teniendo en cuenta además que se realizan por parte de representantes institucionales

del gobierno vasco y del partido como decía que sustenta al gobierno el consejo general del poder judicial

de la mesura que se supone a los dirigentes políticos

por el obligado respeto institucional que se debe presidir las relaciones entre los poderes públicos

a los dirigentes nacionalistas de este gobierno con el lehendakari a la cabeza

no los respetan porque obviamente y valga la redundancia en sus críticas

respeto institucional y esa mesura que debería acompañar a las críticas o acaso es mesura cuando se hacen declaraciones por parte del señor urkullu por parte del señor erkoreka que se hace referencia

es siempre que hay una decisión judicial una resolución judicial una actuación del ámbito de la justicia que no les gusta que no les agrada que no satisface sus intereses cuando ustedes hablan de ajudiciación de la política de la politización de la justicia me mira el lehendakari como si estuviera diciendo cosas muy raras no estas cosas las dicen ustedes

puntual cuando usted mismo dijo que resultaba curioso que todo el procedimiento saliera a la luz en un proceso preelectoral me estoy refiriendo al caso de miguel usted ha hecho estas declaraciones cuando se conoció ya el auto del juez correspondiente al caso

de deslegitimar también la acción de la justicia y habla simplemente de quiebra de las garantías

que no son de su agrado o que no les convienen o que no le satisfacen como decía anteriormente

de la comisión de investigación del parlamento vasco también en un intento de desprestigiar la actuación de los jueces que estaban instruyendo

esta causa por lo tanto como queda patente no es la primera vez señor lehendakari parece ser que es la tónica habitual de un partido de sus diversos dirigentes representantes representantes institucionales cuando intuyen que las decisiones judiciales no

bien por lo tanto son declaraciones que intentan arremeter contra la división de poderes contra la independencia judicial y la independencia judicial

democrático y precisamente esa independencia de los tribunales de justicia que ustedes siempre atacan siempre cuestionan es precisamente la salvaguarda de nuestros derechos y libertades argi dago deklarazio guzti hauekin

es que hay que recordarles porque hay que recordárselo que la justicia no está para satisfacer sus intereses y sus exigencias y que parece ser que los máximos dirigentes políticos institucionales

y como decía no de forma puntual sino reiterada a quienes investigar y tratan de esclarecer la verdad como en este caso

se han producido numerosas declaraciones que intentan como decía deslegitimar desprestigiar los tribunales la acción de los tribunales de justicia

yo no sé si se cree el partido nacionalista vasco que su influencia puede llegar hasta controlar

a tenor de las declaraciones que se realizan parece que quisieran ese control y que los propios tentáculos del ebb llegan hasta los mismísimos tribunales por lo tanto yo les diría que basta ya de críticas desde luego la interpelación y esta iniciativa presentada hoy para debate en esta cámara pretende llamarles

y decirles claramente que basta ya de críticas que intentan atacar al sistema judicial la acción de la justicia cuando

o decisiones que incluso tratan de esclarecer esa verdad que parece ser que ustedes no quieren que se esclarezca por eso en esta

respetar el funcionamiento de nuestro estado de derecho cosas muy básicas cosas muy básicas que parece que hay que recordarle otra vez

como es no interferir en la actuación del poder judicial mediante manifestaciones que puedan desprestigiar y presionar la acción de la justicia eso es lo que pretendía esta iniciativa vistas las enmiendas quiero decir que obviamente no hay aproximación posible

sectario fuera de lugar y que no compartimos en absoluto

que la enmienda del partido nacionalista vasco pues casi parecida

debe preservar siempre todos los derechos y libertades fundamentales de las personas pues sí claro que sí pero aquí

echamos de menos desde luego no ya una autocrítica sino hacer una apelación

en la moción o cuestiones también esenciales que han recogido otros grupos como son el partido socialista el partido de upyd con los que ha sido posible

de transacción es decir como decía el respeto a nuestro estado de derecho no interferir en la actuación del poder judicial también que se puedan hacer críticas como no claro que se pueden hacer críticas

de expresión pero en esas críticas todos los representantes institucionales y ahí incluimos a los representantes institucionales con responsabilidades de gobierno y aquí

como pueden ser portavoces o dirigentes cualificados de los partidos

a que cuando esas críticas se hagan en ejercicio de esa libertad de expresión

judicial nos parece también oportuno una referencia que hace el partido socialista a reforzar los principios de actuación recogidos en el código ético

presente y por lo tanto también es conveniente que se refuercen los principios de actuación recogidos en este código ético referidos al respeto institucional y personal

no se recurra al insulto y la descalificación y luego una cuestión que se la recordamos también de forma habitual a este gobierno que es el cumplimiento de los mandatos parlamentarios acordes con la legalidad vigente y también con las recomendaciones aprobadas por las comisiones de investigación en esta cámara que hay muchas de ellas obviamente que no le gustan a este gobierno

que se aprueban las resoluciones y las recomendaciones correspondientes pues este gobierno debería de cumplirlas o poner los medios necesarios para su cumplimiento

y por lo tanto creo que en la enmienda de transacción se ha recogido

mínimo común denominador y un punto en común en recordar unas cuestiones muy básicas a este gobierno y en ese sentido pues ha firmado esta enmienda de transacción que se someterá a

si esos principios básicos de actuación en la política lo suscribe el partido nacionalista vasco o no yo sin más también agradecer

la posibilidad de haber llegado a un acuerdo con el partido socialista y upyd quiero decir que es un acuerdo que nos satisface yo creo que a los tres y veremos cuál es el resultado de la votación y cuál es la posición del partido que sustenta al gobierno besterik gabe eskerrik asko

bien esperamos no sin un poco de temor a asistir

formulación dispositiva a pesar de esa rectificación que se hizo por parte del proponente y a tenor de las enmiendas de totalidad presentadas puede resultar falaz quizá un poco engañoso un poco escapista y esperamos también

al que debe ser el verdadero objetivo de la iniciativa que entiendo que no es otro que la reivindicación del respeto interinstitucional

la representante del pp partía de una serie de afirmaciones realizadas por un representante del partido que apoya al gobierno y ese punto de partida al final resultó ser exactamente el centro nuclear de la interpelación lo que permitió si se me permite la expresión al portavoz del gobierno escaquearse del pronunciamiento que se pretendía con la interpelación y lavarse las manos como poncio pilatos pero eso ya es una cuestión

sí hubo un representante del único grupo que apoya al gobierno que es el grupo nacionalista y único grupo de esta cámara que no respaldó las conclusiones

de miguel que hizo unas declaraciones claramente despectivas de la labor judicial y esto señorías

también la expresión es aparte de mezquino una señal inequívoca de inexistencia de ciertos déficits democráticos esenciales

no lo es únicamente respecto de la cuestión de fondo o porque no

sino porque las conclusiones judiciales de la fase de instrucción coinciden plenamente el relato parlamentario y eso hay veces que al gobierno le molesta y esto además sin duda viene a demostrar que aquella comisión de la pasada legislatura actuó con rigor que las competencias sustanciadas y la documentación recopilada tenían entidad desde el punto de vista tanto jurídico como político y no como ese mismo representante insistió en denunciar que era un complot político con intenciones

es un recurso fácil que utilizan a menudo desde el partido nacionalista vasco y desde el gobierno cada vez que quedan en minoría en una minoría incomoda todo tiene un trasfondo electoralista y como muestra señorías botones

el rechazo a la ley de administración pública es electoralista la aprobación de la ley de vivienda es electoralista

es electoralista no es el resultado del acuerdo del consenso y del interés en la consecución del bien común es electoralista pero voy a volver al asunto

estrictamente de conformidad con lo estipulado por el reglamento de esta cámara sin interferir de manera ninguna en la jurisdicción sin interferir en los actos de investigación e instrucción que

y pudieran tener relevancia desde el punto de vista penal que es lo obligado y un inciso

que quiera eliminar las comisiones de investigación solo tiene una vía y es interponer y proponer la pertinente reforma parlamentaria y paralelamente señorías volviendo al núcleo

y por lo tanto hay una evidente coincidencia entre las personas llamadas a declarar por el juzgado y las citadas por la comisión

en la documentación manejada por unas y otras instancias y en consecuencia señorías hay una evidente coincidencia entre las conclusiones judiciales y las parlamentarias y aunque parezca de perogrullo el gobierno está obligado

y también debe acatar lo que dice este parlamento

ambos cada uno en su ámbito y del resultado de las actuaciones podrán derivarse responsabilidades penales si así lo decidieran finalmente los tribunales y también podrán derivarse responsabilidades políticas pero sobre todo lo que tocará

para impedir que algo así vuelva a ocurrir eso es lo que tocará

a nuestro grupo por tanto nos parece que lo más constructivo que puede salir de aquí es volver a recordar a perogrullo y recordar al gobierno que debe respetar

los mandatos parlamentarios todos los mandatos parlamentarios que sean acordes con la legalidad vigente y con las recomendaciones

así como con las resoluciones judiciales y esto para no despistarnos y puestos a recordar también hay que recordar cuestiones fundamentales

no es quien debe decir lo que debe hacer el gobierno con el partido que le apoya como se recogía en la literalidad de la moción inicial a pesar de la rectificación

nosotros sí podemos volver a recordar esos compromisos adquiridos esos compromisos adquiridos por el propio gobierno y por el grupo que lo sustenta en esta cámara y esos compromisos que nosotros deducimos son compromisos solidarios entre gobierno y el partido nos estamos refiriendo ético a sus principios a las apelaciones al respeto institucional y personal de forma que todas las opiniones todas las opiniones todas

no puedan ser ni trasladadas ni entendidas como un insulto o una descalificación denunciar la incidencia entre las conclusiones judiciales

dando entender que el juez no ha hecho su trabajo en la forma en la que debe es cuando menos

lo he dicho y lo vuelvo a repetir señorías es quedó demostrado absolutamente

de investigación de este parlamento actuó con absoluto rigor en cualquier caso es una buena ocasión como siempre cualquiera es buena

expresión y cuando digo nuestra digo efectivamente la de todos porque entre otras cosas entiendo que es la mejor manera que se me ocurre para dignificar

cuál es nuestra responsabilidad institucional porque en realidad la tenemos todos quienes gobiernan y quienes no hay que decir también que las negligencias errores de apreciación o de valoración torpezas o incluso intencionalidades políticas que pudiera

en las decisiones judiciales tienen su propio mecanismo de reproche jurisdiccional que si no cabe denuncia recurso o cualquier otra medida de impugnación contra cualquier resolución de un tribunal se pueden exponer siempre discrepancias legítimas pero lo que no se puede hacer nunca y es donde está el límite es cuestionar la propia función de los tribunales así que para finalizar señorías en esta extraña moción

los socialistas preferimos quedarnos con una reiteración expresa de principios y una apelación también expresa

está tentado o alguien pudiera pensar que está tentado

las decisiones judiciales por la vía que sea incluso con

de portavoces interpuestos obviamente señorías vamos a votar esta enmienda de transacción que hemos firmado con el grupo

como digo a todos y a cada uno de nosotros

de los miembros de las instituciones hace una mención expresa al respeto a los códigos éticos no solo del gobierno sino a los códigos

con independencia de que haya dos grupos que no hayan votado esta enmienda entiendo que es perfectamente asumible por todos ellos y pido el respaldo

gracias presidenta la señora garrido nos

al gobierno vasco a respetar el funcionamiento de nuestro estado de derecho

del poder judicial mediante manifestaciones que puedan desprestigiar y presionar la acción de la justicia

refiere a las declaraciones realizadas por determinados representantes del partido nacionalista vasco y del gobierno vasco en relación a las actuaciones de la justicia en el caso de miguel

se habló hace aproximadamente mes y medio cuando otro miembro del grupo popular en este caso el señor carmelo barrio presentaba una moción para

al ejecutivo que figuran en el dictamen de la comisión especial de investigación de

etcétera lo cierto es que cuando se debatió este

que este parlamento rechazara las inaceptables declaraciones

del partido nacionalista vasco contra las actuaciones de la justicia en el caso de miguel declaraciones realizadas con el único y antidemocrático propósito de presionar y condicionar

esta cuestión nosotros quisimos ya hablar debatir y acordar hace mes y medio pero lo cierto es que el resto de grupos especialmente el grupo popular prefirió posponer debate y provocar por lo tanto una duplicidad parlamentaria como consecuencia de aquella decisión estamos hablando hoy de algo de lo que se podía haber hablado

expliqué en aquel debate yo decía en aquel caso que la moción planteada por el señor barrio estaba bien

decía yo y creo que esto es poca cosa conociendo lo que conocemos a día de hoy sabiendo lo que ha ocurrido o algunas cosas de las que han ocurrido y habiendo conocido también y habiendo escuchado algunas declaraciones absolutamente lamentables e inaceptables realizadas por altos diligentes del partido nacionalista vasco en relación a esta cuestión

incluir este asunto en aquella enmienda de transacción para no tener que reiterar posteriormente debates como es lo que se está produciendo a día de hoy y eso es lo que yo preguntaba en aquel momento yo decía para qué vamos a posponer debates este parlamento tiene que tener la suficiente agilidad

tratando de condicionar a la justicia son absolutamente impresentables

y ya había posibilidad de debatir y acordar y votar sobre la cuestión sin embargo en fin no se quiso que esto fuera así y finalmente

en relación a esa cuestión concreta finalmente fue el grupo popular quien realizó una interpelación y de esa interpelación esta moción lo cierto es que

nos parece que son absolutamente impresentables absolutamente

no tenía otro propósito que defender a los suyos e interferir condicionar también las actuaciones judiciales y esto es algo que quedó evidenciado en aquellos días y en aquellas semanas el partido nacionalista vasco en lugar de decir

comportamientos son absolutamente inaceptables y deben ser desterrados de la vida política en lugar de mandar un mensaje contundente contra la corrupción política

es criticar la acción de la justicia y ciertamente esto es algo

lamentable y efectivamente en aquella ocasión el señor barrio me daba la razón me decía que sí que es verdad pero que era mejor debatir solo sobre esto más adelante y aquí nos encontramos debatiendo sobre la cuestión mes y medio después

a los miembros del partido nacionalista vasco aunque esto también vale para el resto de grupos políticos esto también vale para el resto de partidos políticos que no es lo mismo decir por ejemplo respetamos las decisiones judiciales y queremos que se aclaren los hechos investigados que en caso de ser ciertos merecen todo nuestro desprecio

que decir que el partido nacionalista vasco lleva cinco años maltratado escrutado y criticado por este tema o decir que hay una evidente manipulación y tergiversación

de euskadi efectivamente no es lo mismo y de las dos formas se puede defender evidentemente la presunción de inocencia de los investigados o de los acusados nosotros preferimos la primera opción criticar determinados comportamientos aunque sean supuestos

criticarlos ser contundente en relación a esos comportamientos y evidentemente si se quiere enarbolar la bandera de la presunción de inocencia sin embargo ya digo que el partido nacionalista vasco lo que prefirió hacer fue

en cuanto a la justicia investiga a determinados miembros de esos partidos políticos o les acusa de determinados comportamientos ilícitos ilegales o se les acusa de determinados comportamientos corruptos lo que la mayoría de los partidos políticos han venido haciendo durante largos años en euskadi y en españa es atacar a la justicia atacar y tratar de condicionarla y este es un comportamiento que debe ser desterrado

y ciertamente el partido nacionalista vasco se ha caracterizado por llevar a cabo este tipo de actuaciones por hacer esas críticas a la justicia por tratar de condicionarla pero no ha sido el único

ha investigado a determinados miembros del partido popular o del partido socialista obrero español o de otros partidos políticos lo que han venido diciendo es

intentado hacer es poner en cuestión la actuación de la justicia y proteger a sus propios cargos públicos o no públicos y esto es algo que debe ser desterrado de la acción política de la vida política vasca y española respetar por lo tanto

acatar las decisiones judiciales se puede criticar evidentemente pero siempre desde el máximo respeto y sobre todo en lo que hay que incidir es en la deslegitimación de esos comportamientos que son absolutamente inaceptables criticarlos siempre no cuando sean comportamientos

a miembros de otros partidos políticos sino también cuando se les acusa a miembros de los propios partidos políticos siempre y esto es algo que efectivamente no se ha hecho

de proceder habitual de la mayoría de los partidos políticos sin embargo aún hay más todos ustedes

o van a hablar de la independencia del poder judicial sin embargo la justicia en españa está profundamente politizada la justicia en españa no es plenamente independiente está politizada es más está colonizada por los principales partidos políticos

y así en fin podemos ver cómo se eligen por ejemplo a los miembros del consejo general del poder judicial y sobre esta cuestión nadie ha dicho nada y nadie quiere cambiar la forma de elección de los miembros del consejo general

no hemos querido plantearlo como un tema

que no iban a aceptar el resto de partidos políticos pero sin embargo consideramos que es un asunto absolutamente esencial en españa la justicia está absolutamente politizada la justicia está politizada y no es independiente porque los partidos mayoritarios quieren que lo esté

despolitizarla y garantizar su independencia los partidos mayoritarios continúan repartiéndose los puestos en función de sus respectivas cuotas consolidando así el desprestigio del órgano de gobierno de los jueces del consejo general

no hay ningún país de nuestro entorno en el que el nombramiento del órgano de gobierno de los jueces corresponda en exclusividad al parlamento por lo tanto esto también

corregirlo y habría que cambiarlo por no hablar de la actuación de la fiscalía que en demasiadas ocasiones ha actuado o actúa como abogado defensor en función de quién sea la persona investigada por lo tanto termino se trata de hacer todo lo posible para luchar contra la corrupción política las corruptelas el amiguismo y el enchufismo se trata de que cuando este tipo de comportamientos prioricemos su deslegitimación lo cual por cierto no es contradictorio con defender la presunción de inocencia de los investigados

de garantizar a través de los mecanismos legales establecidos de las reformas que sean necesarias la independencia de la justicia respecto del poder político porque sin ella sin una justicia verdaderamente independiente no hay democracia plena y hoy en españa la justicia está profundamente politizada eso también hay que cambiarlo no basta con criticar por lo tanto al partido nacionalista vasco

esto también hay que cambiarlo y los partidos políticos ciertamente no han querido
y siguen sin querer llevarlo a cabo gracias eskerrik asko maneiro jauna

bai egun on guztioi es curioso asistir a una petición de separación de poderes en un estado en el que la politización de la justicia se da desde el momento de la conformación de las principales

y camarillas políticas es cuestionable que se exija un compromiso al gobierno en relación a temas como la corrupción y no se haga lo mismo con los casos políticos con los secuestros de jóvenes vascos por parte de la policía autóctona o extranjera

existen dos ámbitos judiciales que hoy ponemos encima de la mesa el social y el político la corrupción política la mala gestión de lo público

hacen de las instituciones su cortijo o su baserri particular otros muchos casos en los que son evidentes esos excesos ni tan siquiera son punibles a nivel legal ya que los mismos que son juzgados son los que han creado unas leyes que les permiten hacer y deshacer a su antojo

o tratarle según su mérito sin atender a otro motivo especialmente cuando hay competencia y disputa aquí radica parte del problema que hoy se debería tratar de fondo y es que la búsqueda de la justicia según rousseau debe estar en la igualdad de las leyes

iguales ante todos y no beneficien a ciertos sectores ni que sean injustas para ello defendía un sistema democrático real

no vamos a poder denunciar desde la ciudadanía la injusticia de las leyes cómo no vamos a poder señalarles con el dedo cuando desahucian al obrero y dejan en la calle a banqueros y corruptos cómo no vamos a denunciar la desigualdad en las penas en la aplicación de las leyes cómo no vamos a poner en duda

ditu esa justicia que defiende la corrupción y penaliza la protesta social esa justicia injusta basada en la legalidad creada para perpetuar un sistema de desigualdades sociales y económicas por otro lado existe una clara y evidente politización de la justicia y que

de la politización de la justicia de su uso como una herramienta más de castigo político contra todas aquellas personas que por su forma de pensar hoy siguen siendo encarceladas en cárceles del estado español jóvenes y no tan jóvenes son sacados de sus casas llevadas ante una justicia que vulnera sus derechos permite las torturas

en vida durante años o décadas y repito su único delito demostrable ha sido el de hacer política y así se desprende de los autos judiciales

hoy el debate se quiere centrar en la primera de las que he hablado en la justicia de carácter más social y yo les diré que por lo menos desde mi grupo seguiremos insistiendo para que los jueces

dejación en sus funciones y todo lo que implique que se continúe robando a la ciudadanía seguiremos yendo donde el fiscal si el gobierno vasco no

si hace falta para entregarle información que nos llegue sobre otros casos de corrupción y le exigiremos que haga su trabajo que sea vehemente con los culpables y que intente conocer

diguzuelako sinesten uzten no creemos porque ustedes no nos dejan creer en un sistema de control público que no permite realizar control alguno en el parlamento y en el que unos y otros se esconden sus vergüenzas

saber nosotros también queremos saber tenemos derecho a saber y aquellos que cometieron la corrupción tienen el deber de pagarlo evidentemente cuando acudimos a la justicia para denunciar estos delitos contra la administración pública no acudimos a una administración de justicia que aprobamos desde eh bildu acudimos a la que hay

pero no tenemos otra que nos defienda de esos delitos que nos aporte verdad y reparación nosotros apostamos por una justicia propia con jueces y juezas naturales de euskal herria cercanos a la realidad de nuestro pueblo y que basen sus decisiones en la interpretación de la realidad social del tiempo

esto último también deberían exigírselo a todos los jueces todos ustedes ya que es parte del código civil del estado español

la que ha sido nuestra enmienda denominada por sectaria lo que creemos

por todos los grupos que se hacen llamar vascos y es que el parlamento inste al gobierno

vasco no politizado compuesto por jueces naturales de contrastado apego a euskal herria y a su ciudadanía y que conforme a valores como la equidad justicia social y respeto y salvaguarda de los derechos y libertades de toda la ciudadanía interprete las normas con arreglo a la realidad de los tiempos en que se deben aplicar

hasta cuándo el furor de los déspotas será llamado justica y la justicia del pueblo

hoy me lo pregunto yo cuando el problema no debería radicar en el cuestionamiento del sistema judicial y sí en las leyes injustas

y que defienda a los poderosos frente al pueblo ustedes en ese caso no quieren entrar al fondo

nosotros y nosotras criticaremos las decisiones judiciales que no sean justas con el pueblo criticaremos las decisiones judiciales

a gobernantes corruptos como los del partido popular en el estado español criticaremos a jueces para los que la igualdad ante la ley depende del poder del encausado criticaremos todo aquello que no sea en verdad justo pero por supuesto que también iremos ante la justicia para reclamarle exigirle y darle toda la información que recaigan en nuestras manos sobre todo los casos de corrupción que detectemos así lo hemos hecho y lo seguirnos haciendo hasta que la justicia y las leyes representen finalmente una democracia igualitaria

y hay una propuesta de enmienda de transacción entre algunos grupos pero

a la iniciativa del partido popular a la que el partido popular presentó en esta cámara

que este parlamento inste al gobierno a respetar el funcionamiento de nuestro estado de derecho

que de hecho la iniciativa la moción original era todavía mucho más interesante porque contenía unas pocas palabras que después han sido

a todo esto que he leído por empezar por algún sitio me gustaría empezar por el concepto de estado de derecho porque siempre me ha llamado la atención el sentido

en los del partido popular muchas veces pero no solamente los del partido popular también en los discursos del parlamentario de upyd y en ocasiones

el pequeño trabajo de leerme unos cuantos debates parlamentarios en los cuales se ha hablado en torno al estado de derecho y de verdad

que casi siempre que invocan el estado de derecho lo hacen en un contexto bien policial o bien judicial que casi siempre lo mencionan como sinónimo de algo así como

y básicamente en ese contexto yo creo que de verdad

no merece en el discurso político una aplicación tan restrictiva

porque no sé si les suena eso que dicen la acepción débil

previamente aprobada es una de las definiciones que se utiliza del estado de derecho por ejemplo hemos visto hace pocos días al primer ministro húngaro argumentar que

tiene un estado de derecho y que por lo tanto reivindica para sí la posibilidad de legislar sobre poner en vigor de nuevo la pena de muerte

que contravenga los principios de la unión europea y me llamó la atención verle invocar

el concepto de estado de derecho que más nos gusta nosotros desde luego preferimos

o sustantiva del estado de derecho y por eso hemos presentado la enmienda que hemos presentado simple y a nuestro modo de ver

social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad importante

y me pregunto por qué el partido popular habla tanto del estado de derecho

su propia constitución española otorga a ese estado de derecho es decir de social y de democrático gauza da

cuánto cuatro o cinco meses que hemos visto a la mitad del gobierno del señor rajoy que creo recordar que es del partido popular criticando

criticándolos de tal forma que unos y otros

cuántos meses hace de esto y quiénes eran una tal soraya sáez de santamaría o un tal catalá un tal jorge fernández no

a lo mejor debía haber sido el grupo popular en el congreso de los diputados el que presentara una iniciativa como la que hoy nos trae aquí a esta cámara instando al gobierno del estado a respetar el funcionamiento de su estado de derecho y a no interferir en la actuación del poder judicial no hubiera estado mal debería haberlo hecho y de paso haber aprovechado la ocasión para recordar lo de losdos adjetivos calificativos de su estado de derecho según su constitución que es social y democrático

pues el grupo socialista o el de upyd lo han hecho

al amparo al cgpj y este se lo denegó

recordar a este respecto que el consejo general del poder judicial lo elige a medias el congreso y el senado que el presidente del consejo general del poder judicial es

es muestra de la separación de poderes también que soraya sáez de santamaría ponga el grito en el cielo

se le detenga de nuevo otra muestra de respeto a la separación de poderes

anunciara la querella de la fiscalía contra mas por haber cometido el gravísimo delito

de hecho los ejemplos de respeto y se pongan comillas a un lado y a otro de la palabra al principio de separación de poderes en el estado español son legión los de la judicialización de la política otros tantos los de la politización de la justicia otros tantos más

el haber llevado al banquillo al lehendakari ibarretxe por ejemplo la

por ejemplo la sentencia del tribunal constitucional si no me equivoco de enero pasado en el cual anula un simple acto declarativo del parlament catalán por el gravísimo delito de lesa majestad de haber declarado el derecho a la soberanía del pueblo catalán

por ejemplo por no hablar de otros muchos ejemplos de respeto con muchas comillas al estado de derecho en su acepción más material y profunda por ejemplo hace poquitos días hemos visto a izaskun bilbao europarlamentaria recordando al consejo de europa o a la comisión europea no recuerdo pues eso a ver lo que significa

sentencias condenatorias por no haber investigado denuncias por torturas

o la que anulaba la doctrina parot o etcétera etcétera todo depende de cómo se entiende el estado de derecho y por cierto y concretando

miembro de su gobierno han ejercido ninguna injerencia de nada en ninguna función judicial lo que en su día dijeron el señor egibar o el señor ortuzar dentro de eso que es su constitución llama derecho básico

mayor relevancia que lo que pueda ser el mero discurso político este parlamento no debería convertirse en censor de las declaraciones de los representantes

ha llevado a ningún juez ni a ningún magistrado de ningún tribunal a solicitar amparo a ningún consejo general del poder judicial

aparentemente a usted le causa tanto escándalo a mi modo de ver es puro postureo esta iniciativa es postureo como otras tantas que se traen a esta cámara

de hecho señor garrido tómese el trabajo de comparar

con el dictamen parlamentario que todos estudiamos en profundidad antes de votarlo no me cabe duda

en el auto judicial dónde dónde dónde aparece el presunto que los señores parlamentarios

introducir en su dictamen eskerrik asko arrizabalaga andrea

pues la verdad que gracias señora presidenta la señora

una vez más iba a decir lo que se suele decir pero obviamente por lo que

desafortunada en el planteamiento de su debate mire lo que se evidencia tras su intervención a parte de corroborar que ya sabemos

y partidista es una visión absolutamente partidista de lo que es el estado de derecho ese estado de derecho que también le salvaguarda a ustedes ese estado de derecho que también

de las personas que están siendo enjuiciadas que han sido imputadas que han sido encausadas en un proceso judicial

es ese estado de derecho que tiene unas garantías las garantías que nos protegen a todos porque eso es el estado de derecho

usted dice que hemos traído demasiadas veces en este parlamento los debates del estado

si es que desgraciadamente en esta tierra y también por la dejación de muchos dirigentes políticos con responsabilidades de gobierno como ha sido el partido nacionalista vasco

muchas veces con muchos planteamientos que ha planteado la izquierda abertzale también y muchos debates en esta cámara

conjuntas otros partidos y entre ellos el partido popular y también otros partidos con representación

iniciativas para defender el estado de derecho

democrática del partido nacionalista vasco así lo haya hecho porque sorprende por eso nos sorprenden mucho las declaraciones

porque hay críticas y críticas y sus críticas siempre pretenden el mismo objetivo y sus críticas

y cuando siempre hay casos que afectan a personas y dirigentes del partido nacionalista vasco ahí vienen las críticas

del partido nacionalista vasco con un objeto y un objetivo muy concreto desprestigiar menoscabar despreciar atacar el poder

debates para poner en valor lo que es el estado de derecho porque en demasiadas ocasiones ustedes han sustentado apoyado discursos que han venido a atacar a ese estado de derecho que por cierto también

en el partido nacionalista vasco por mucho que les molesten porque aquí la justicia es para todos esa es la garantía de un estado de derecho que la justicia es igual para todos y también es igual y también puede afectar a casos de corrupción que pueda afectar al partido nacionalista vasco

qué quiere que le diga que personas relevantes del partido nacionalista vasco puedan estar imputadas y vaya a abrirse el juicio oral en el caso de miguel con personas que han tenido responsabilidades y vinculadas al partido nacionalista vasco pues tendrán que ser juzgados como están siendo juzgadas personas

pues es que la democracia el estado de derecho es así por lo tanto vuelvo a decirle

partidista sectaria de que lo que es la política de lo que es el estado de derecho de concepción de país es que ustedes

y se creen que el país es suyo que ustedes pueden controlar a los jueces que ustedes pueden decir aquí lo que que no que no que ustedes no pueden decir lo que les da la gana que euskadi es plural

porque el partido nacionalista vasco parece que se quiere apropiar de todo por eso yo creo

influir en las resoluciones de los tribunales de justicia pues no no

pues obviamente hay resoluciones judiciales que no les gustarán y se tendrán que aguantar es que esto viene a colación es que el señor egibar se despachó diciendo y arremetió contra el juez

es que el señor egibar y los dirigentes del partido nacionalista vasco y de este gobierno

el buen trabajo que se había hecho en una comisión de investigación y efectivamente que el juez al final llega a la misma conclusión que el parlamento vasco no llegan a la conclusión contraria qué casualidad

nosotros hoy aquí con el acuerdo que hemos alcanzado le volvemos a recordar a este gobierno las premisas básicas de lo que

al partido que sustenta al gobierno eta bakarrik

gracias presidenta de nuevo buenos días señorías de nuevo efectivamente y como ya sospechábamos el debate ha sido escapista y ha transcurrido por

que van en este caso alejándose torticeramente del núcleo de la cuestión y del objeto del debate y van desde la politización de la justicia ordinaria

estoy hablando de jueces de instrucción hasta la concepción metafísica y metajurídica

pero en cualquier caso señorías lo que sí ha quedado claro es que yo creo que todos estamos de acuerdo a pesar de que no nos guste reconocer que

pero sobre todo los gobiernos y los representantes de los partidos que sustentan al gobierno por su plus de responsabilidad

respetar las actuaciones no solo judiciales

sino también del resto de los organismos e instituciones públicas la señora garrido tenía razón no se puede decir lo que a uno le sale por la boca no se puede decir lo que a uno le da la gana no se puede eso no es libertad de expresión y si queremos dignificar la política queremos que los ciudadanos no nos traten y puedan decir de nosotros lo que quieran que ellos sí pueden

es respetar cada una de las instituciones en las que no participamos y respetar a cada uno de los representantes con los que no compartimos todo

la única manera de por lo menos ser

que buena falta nos hace y entiendo que al gobierno le hubiera faltado un poquito de humildad y reconocer o al gobierno o al partido que lo sustenta reconocer

es perfectamente legítima pero menospreciar la actividad o la actitud en la actividad o en el ejercicio de sus funciones de cualquier otro representante o de cualquier otro representante no político sino también de cualquier otro de los poderes del estado es

y además desprestigiar la propia actividad de quien lo hace

el problema es que todos creemos que tenemos la razón y efectivamente parece que es así porque la razón debe ser lo que mejor

y más repartido está en este mundo todo el mundo está convencido de que la tiene pero como no resolvamos y empecemos a entender que la razón de algunos no tiene por qué ser contraria a la razón de otros

que diciendo burradas no vamos a conseguir absolutamente nada yo creo que la enmienda transaccional que hemos firmado

apela a que todos y cada uno de los representantes

y al gobierno también porque firmó un código ético y entendemos que su partido también apela como decía a que lo cumplan y a que entre todos terminemos por fin de hacer algo para prestigiar no solamente nuestro propio trabajo sino la propia realidad política social

absolutamente nada va a seguir defendiendo como lo ha hecho

a mí me parece bien que usted critique determinadas declaraciones

por altos representantes del gobierno de españa o que usted critique las declaraciones realizadas por altos representantes del partido popular y del partido socialista obrero español que critiquen lo que han venido haciendo durante los últimos tiempos y que efectivamente denuncie que ellos también

la acción de la justicia me parece bien es correcto pero es que a continuación después de criticar esas declaraciones después de criticar esos comportamientos lo que usted ha dicho es que las declaraciones realizadas por el señor ortuzar y el señor egibar en relación a esta cuestión son perfectamente razonables otra vez estamos con lo mismo defendemos a los nuestros en función de los intereses nuestros de nuestros propios intereses ese es el asunto que hay que corregir

por lógica y sentido común por coherencia lo que tiene que decir es que también fueron inaceptables las declaraciones realizadas por el señor ortuzar y por el señor tratando de condicionar la acción de la justicia y defendiendo a los miembros de su propio partido que están siendo investigados por la acción de la justicia por lo tanto insisto lo que ustedes lo que el partido nacionalista vasco y lo que el gobierno tenía que haber dicho es que esos supuestos comportamientos son absolutamente inaceptables

y que hay que acabar con ellos y a continuación pueden evidentemente defender la presunción de inocencia pero lo que

es decir que esos comportamientos son inaceptables y tenían que haber dicho que van a perseguir esos comportamiento y que la corrupción el enchufismo

todo eso hay que desterrarlo y eso es lo que no hizo el partido nacionalista vasco todo lo contrario estamos ante un caso de supuestas

y actuaciones ilegales y de corrupción política y ante eso lo que hizo el partido nacionalista vasco es atacar a la justicia dijo que no se han garantizado ni se han protegido las garantías judiciales atacó al fiscal jefe

dijo que había un interés electoral en perseguir al partido nacionalista vasco todo esto es lo que dijeron que lleva cinco años maltratado escrutado y criticado el partido nacionalista vasco por este asunto que hay una evidente manipulación y tergiversación para dañar la imagen del partido nacionalista vasco todo esto es lo que efectivamente dijeron

como usted misma ha reconocido pero es que en lugar de criticar esas declaraciones lo que a continuación dice es no

declaraciones absolutamente razonables si las hubiese hecho cualquier miembro de cualquier otro partido político usted las habría criticado

como el partido popular en cuanto miembros de estos partidos políticos han sido investigados por casos de corrupción política lo que han venido haciendo

verdadero asco a la sociedad española es que han preferido proteger a los suyos y atacar a la justicia este no es un comportamiento

al partido nacionalista vasco lo han practicado otros partidos políticos y es lo que yo he venido a denunciar nosotros hemos respetado siempre la acción de la justicia eso sí hemos llevado a cabo iniciativas políticas y judiciales para perseguir a los corruptos eso si que es algo a lo que nos hemos dedicado

ocho años de vida de upyd cero corruptos cero acusados por corrupción política cero investigados por corrupción política ese es el bagaje nosotros por lo tanto no hemos tenido que defender a ninguno de nuestros miembros ante la acción de la justicia ustedes sí lo han hecho reiteradamente y no solo el partido nacionalista vasco también el resto de partidos políticos y estaría bien que usted lo reconociera porque si son inaceptables las declaraciones de determinados miembros del psoe y del pp también son inaceptables las declaraciones del señor

y efectivamente hay que perseguir esos comportamientos y hay que denunciar esas declaraciones y hay que poner en marcha medidas

legales y de todo tipo para despolitizar la justicia algo que por cierto nadie ha comentado en este debate a pesar de que he hablado de la cuestión

en españa la justicia en españa está politizada el consejo general del poder judicial está ocupado por los principales partidos políticos

se han negado permanentemente a sacar sus manos

en fin compórtense respeten a la justicia deslegitimen a los corruptos persigan la corrupción y en fin saquen sus manos
también de la justicia y en concreto del consejo general del poder judicial eskerrik asko maneiro jauna esto es lo que debería hacerse eskerrik asko

sí para algunos y algunas de nosotros la democracia no es simplemente una figura

ejercerla y eso es lo que le da virtualidad eso es lo que le da realidad eso es lo que la ciudadanía demanda no simplemente

que es lo que es para el partido popular si la democracia se tiene que defender únicamente desde el poder judicial es que existe un problema real en ese estado

desde el poder judicial dice mucho de cuál es el carácter democrático del estado español y dice mucho también de cuál es el carácter democrático del partido popular

la justicia no es igual para todos y todas en el estado español vuelvo a repetirle existe una justicia que no es igual para los poderosos que para los pobres una justicia que no es igual para sus políticos y para el resto de los políticos y una justicia

para sus corruptos para el resto de los corruptos de los partidos amigos suyos y para las personas

de poder del partido popular del partido socialista obrero español esa justicia por otro lado es la misma que a través de tribunales de excepción políticos puramente políticos encarcela y secuestra a militantes políticos

esa justicia es la que no deja avanzar la democracia en el estado español esa justicia es la que ustedes manipulan es la que ustedes parasitan es la que ustedes presionan y es la que se señala desde europa

como algo a acabar con ello con esos ejemplos de manipulación jurídica y es que ustedes dicen la separación de poderes en el estado español

está a la par de irán datos por detrás de

india y la china popular también con lo cual poner de ejemplo de la separación de poderes al estado español

pura mentira puro faranduleo ustedes son y ustedes parasitan la justicia antes el señor maneiro no me ha debido de escuchar pero creo que la crítica a la politización de la justicia que he realizado en mi primer discurso ha sido bastante claro y la denuncia ha sido bastante contundente

que nos ocupaba hoy decía

políticos evidentemente de ninguno pero cuando este mismo o los representantes del gobierno salen a criticar las declaraciones que realizamos que han realizado otros representantes políticos del parlamento tampoco entiendo que no debería ser censor ni sus opiniones deberían censurar lo que aquí se dice o intentar censurarlo también se decía que las críticas que podía realizar el señor

o no habían sido de recibo estoy de acuerdo no creo que sean unas críticas que se puedan

a través de acuerdos parlamentarios en los que se han a través de un análisis una auditoría digamos de lo que sucedió como pudo ser el caso de miguel o como pudo ser el caso

que fueron votadas por la mayoría de este parlamento y esas conclusiones se pusieron también en duda políticamente

las decisiones de este parlamento es poner en duda la propia justicia ordinaria que

es la única a la que podemos acudir en casos de corrupción y a la que acudiremos y seguiremos acudiendo desde euskal herria bildu y es la única que tenemos

creemos que el debate de hoy debería haber girado en torno a otras cuestiones y también diremos para acabar

de derecho y social y democrático en ese estado el señor rajoy

deberían estar condenados por crímenes sociales eskerrik asko lópez de munain jauna

a mí me gustaría poner de manifiesto la dicotomía que ha expresado

judicial o la justicia me ha parecido bastante clarificador y supongo que al hilo de alguna crítica que le hacía en algún debate previo ikaragarriak

portavoz del partido socialista señora gallastegui ha hablado de metafísica

es una palabra adecuada es algo parecido a lo que he pensado que es la enmienda de transacción que

ha sido firmada porque si no es metafísica cuando menos vamos a hablar que son conceptos jurídicos indeterminadísimos entre otras cosas como obviedades y que desde luego hay alguna frase que pretende

a la opinión ajena que jurídicamente no sé si es metafísica pero realmente difícil

que la opinión no pueda ser entendida como insulto o descalificación no sé si se refiere a condicionar a las personas concernidas por ese código ético

difícil o si se está refiriendo a condicionar la forma de interpretar esas palabras que puedan hacer otras personas ajenas a las concernidas por el propio código ético lo que

antes lo he dicho y lo vuelvo a repetir y esto se lo digo a la señora garrido del partido popular me parece una iniciativa pues eso de postureo político y frívola

importante yo no diría que metafísico como el del estado de derecho como excusa para traer a esta cámara y volver a renovar

tema que les interesa de vez en cuando y no olvidemos que la interpelación se produjo

antes de las elecciones municipales pues de los supuestos casos de corrupción eso

mantener bailando en la pista del circo y para eso

frivolizan con conceptos que son mucho más serios que todo eso y

yo he dicho que los propios jueces y magistrados pidieron amparo a cuenta de esas críticas y a lo mejor lo que digo es que el partido popular la señora laura garrido ve

todas estas cuestiones en aquella intervención parlamentaria en cuanto al buen trabajo que se hizo en la comisión de investigación de esto ya hablé en la anterior ocasión

desde luego no me acordaba pero me han hecho recordar lo de que

se produjo una coincidencia esta sí que debe ser metafísica o cósmica con las conclusiones del auto judicial y el tema de los expertos en derecho que éramos y luego

creo que hemos hablado mucho y el tema de que soy sectaria y partidista y la presunción ah y lo de la dejación del partido nacionalista vasco y la cierta connivencia con la izquierda

lo cierto es que el señor lehendakari hace algunas semanas vino a decir algo así como que la legislatura del señor rajoy

y me sorprendí porque estaba de acuerdo en este caso con el señor lehendakari yo creo efectivamente que hay que proceder a una reforma

el estado para hacerlo más viable para garantizar que haya más igualdad más solidaridad y defender en última instancia los intereses del conjunto de la ciudadanía evidentemente ya sé que el señor lehendakari no pretende alcanzar esos objetivos sino defender sus propios intereses como nacionalista pero estoy de acuerdo en que efectivamente hay que proceder cuanto antes a una reforma constitucional para reformar modernizar y actualizar

el estado y eso es lo que nosotros hemos señalado y recogido en esta moción que hemos registrado digamos que esta moción recoge la esencia de lo que en opinión de upyd debe hacerse

en los próximos tiempos para alcanzar esos objetivos evidentemente no va a ser fácil evidentemente nos encontramos ante un cambio político de alcance evidentemente en los próximos meses vamos a tener seguramente un congreso de los diputados con muchas fuerzas políticas diversas y que por lo tanto va a ser muy difícil alcanzar los acuerdos necesarios para proceder a esas reformas pero yo creo que son indispensables llevarlas a cabo con el máximo consenso con la participación del mayor número de partidos políticos

y creo humildemente que finalmente se terminará haciendo porque es indispensable para hacer del actual estado un estado viable más eficaz y que sirva para atender mejor al conjunto de los ciudadanos españoles y en esa moción hemos recogido

lo fundamental de lo que en nuestra opinión debe hacerse por eso proponemos que este parlamento inste

a impulsar a través de los procedimientos legales establecidos como no podía ser de otra manera

y constitucionales que sean necesarias a fin de promover un estado federal simétrico y solidario conformado por comunidades autónomas todas ellas con las mismas competencias se clarifique y cierre la distribución de competencias entre estado comunidades autónomas

asuma el estado una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias clave y se supriman todos aquellos privilegios fiscales o financieros ahora existentes todo ello porque este es objetivo fundamental para garantizar la viabilidad del estado

del conjunto de los ciudadanos y proponemos que este parlamento recuerde que cualquier decisión sobre el modelo territorial del estado y la propia constitución como se sabe y como no podía ser de otra manera al conjunto de los ciudadanos españoles y debe llevarse a cabo obviamente a través de los procedimientos legales establecidos

al nacionalismo vasco no he venido digamos a criticar cuáles son sus objetivos es legítimo que cada partido político trate de alcanzar sus propios objetivos lo que cada partido político considere que debe hacerse en euskadi o en el conjunto de españa yo lo que aquí pretendo hacer es señalar

aquello que debe hacerse en opinión de upyd para beneficiar al conjunto de los ciudadanos españoles cada partido político tendrá su propuesta tendrá su modelo tendrá sus aspiraciones sus objetivos nosotros señalamos aquí y voy a proceder a explicar qué es aquello que en nuestra opinión debería hacerse es difícil llevar a cabo estas reformas pero creo que el arte de la política debería ser

aquello que es necesario y todas estas medidas que voy a proponer creo que son necesarias por cierto cada vez se habla más de ellas

cosas en fin tan supuestamente disparatadas como la supresión del concierto económico

como la supresión de las diputaciones provinciales y también de las forales como la fusión de municipios yo aquí desde hace seis años vengo defendiendo la reforma de la constitución española y tengo que decir que en los últimos tiempos cada vez hay más ciudadanos cada vez

que está hablando de estas cuestiones y esto está bien que haya cada vez más gente que haya cada vez más partidos políticos estas cuestiones hoy ya no es raro hablar en euskadi de la necesidad de garantizar la máxima igualdad para el conjunto de los ciudadanos vascos

una misma fiscalidad para el conjunto de los ciudadanos vascos hoy en euskadi ya ni siquiera es raro y proponer la fusión de municipios o la supresión de las diputaciones forales es una posición minoritaria cierto es una posición supuestamente minoritaria cierto pero no es raro porque ya ha estado aquí upyd dando la tabarra sobre estas cuestiones

tanto en euskadi como en españa y creo que lo que un partido político tratar de hacer es que determinadas iniciativas que creo que son buenas puedan salir adelante y tengan cada vez más apoyo por lo tanto

y las medidas a tomar para modernizar españa para reducir las triplicidades o duplicidades existentes acabar con el gasto superfluo y las ineficiencias y el gasto superfluo absolutamente innecesario para garantizar más igualdad y más solidaridad para hacer más viable y eficiente el estado y el conjunto de las administraciones públicas

a lo importante al conjunto de la sociedad para garantizar más y mejor educación más y mejor sanidad

para destinarlo a las inversiones realmente productivas para destinarlo al gasto social para destinarlo a la dependencia para destinarlo a la creación de empleo

atender las necesidades reales de la ciudadanía el dinero público no puede destinarse a sostener instituciones que son absolutamente innecesarias o para mantener entes duplicados y triplicados que nos cuestan un ojo de la cara

inversiones que no son en absoluto necesarias y mucho menos productivas el dinero público no puede destinarse a fomentar o a proteger cosas como el deporte profesional debe destinarse a lo realmente importante

son absolutamente indispensables hay que reformar el modelo de estado hay que reformar la constitución española hay que alcanzar un estado federal simétrico y solidario conformado por comunidades autónomas por cierto seguramente menos de las existentes o sin ninguna duda menos de las existentes

competencias debemos tener cuatro niveles institucionales europa gobierno de españa comunidades autónomas y ayuntamientos tenemos que proceder a una redistribución y clarificación de competencias para que no existan tantos conflictos competenciales como a día de hoy existen

gestionadas obviamente por las comunidades autónomas tenemos que proceder a la supresión de las diputaciones provinciales esto nos supondría un ahorro

millónes de euros las diputaciones provinciales son entes

absolutamente antidemocráticas porque no hay elección directa se han convertido en agencias de colocación son extraordinariamente caras y además dejarían de ser necesarias si se llevara a cabo el procedimiento de fusión de municipios y cosa parecida en relación

consideramos también que son innecesarias y que son caras y que habría que proceder a una distribución de competencias distinta donde también tendrían que tener muchas competencias los ayuntamientos fusionados hay que proceder por lo tanto también a la fusión de municipios existen en españa más de ayuntamientos y en euskadi doscientos cincuenta y uno con el objetivo de prestar mejores servicios a los ciudadanos para poner en marcha economías de escala se puede hacer y se ha hecho

según el consejo de europa en los últimos años la mayor parte de los países redujeron notablemente el número de municipios bulgaria el ochenta y ocho por ciento

pasando de dos mil doscientos ochenta y uno a berrehun eta laurogeita sei dinamarca el ochenta por ciento

a doscientos ochenta y cinco bélgica el setenta y ocho por ciento

algo menos de seiscientos reino unido el setenta y seis por ciento pasando de dos mil a algo menos de quinientos alemania el sesenta y siete por ciento

a ocho mil chequia el cuarenta y cuatro por ciento pasando de once mil a sei mila austria el cuarenta y dos por ciento pasando de cuatro mil

pasando de setecientos cincuenta a cuatrocientos y holanda el treinta y seis por ciento pasando de mil

han llevado a cabo este proceso de fusión de municipios en euskadi y en españa también es necesario y antes o después se hará

indispensable hay que garantizar también la máxima igualdad fiscal en este parlamento es habitual que distintos partidos políticos defiendan

para el conjunto de los ciudadanos vascos y mismos servicios públicos para el conjunto de los ciudadanos vascos estamos de acuerdo queremos trasladar este principio al conjunto de españa misma fiscalidad mismos servicios mínimos

podría tener el margen correspondiente para incrementar o reducir los impuestos y obviamente elegir cada una de ellas sus propias prioridades en fin esto es lo que creo que debemos hacer y desde luego también aquí habría que reformar

y habría que proceder a reformar o directamente suprimir la ley de territorios históricos por lo tanto defendemos un estado unitario

un estado federal simétrico y solidario y en este punto podemos admitir que pueden existir determinadas asimetrías que pueden ser aceptables y que no están puestas a día de hoy en cuestión como puede ser la propia existencia

y no provoca digamos mayor problema hay otras asimetrías que en realidad no son asimetrías es decir que determinadas comunidades autónomas tengan determinadas competencias en función de sus características propias como pueden ser la insularidad esto consideramos que no son o no pueden ser consideradas asimetrías pero luego hay asimetrías que no son aceptables como puede ser el mantenimiento del concierto económico

tomaría sus propias decisiones dinero más dinero o menos para sanidad más o menos dinero para educación o en fin televisión autonómica en función de lo que decida cada comunidad autónoma pero en todo caso se trata de tener las instituciones necesarias y una distribución de competencias razonable que garantice la máxima igualdad posible por tanto un estado lo que proponemos

más igualitario más transparente más ligero mejor dispuesto y más disponible las necesidades reales de los ciudadanos más eficaz más útil y mejor para todos y además de esto habría que hacer alguna cosa más y ya termino habría que acabar con la corrupción política la corrupción política nos supone

reciente realizado hay que acabar también con la mala gestión ahí tenemos el ave mal estructurado o los aeropuertos

o las carreteras sin coches hay que acabar con el derroche y el despilfarro hay que reducir entes y empresas públicas absurdas que no sirven más que para que cada partido político

hay que impulsar reformas de todo tipo reformas también

para que haya más transparencia más participación ciudadana más democracia y desde luego más y mejor diálogo político como decía antes la política es el arte de hacer posible lo que es necesario creo que

es perfectamente necesario y creo y deseo que todo esto cuanto antes pueda llevarse a cabo es lo que interesa al conjunto

el debate que hoy nos ocupa no es precisamente nuevo en esta cámara lo hemos tenido en muchas ocasiones y supongo que en un futuro no muy lejano lo tendremos muchas más

señor maneiro pensamos que no es un debate que debamos afrontar a golpe de moción buscando un momento de protagonismo con las posturas particulares de cada cual

es un acuerdo difícil es un acuerdo trabajoso es un acuerdo muy importante y muy difícil sobre un asunto que especialmente aquí en euskadi

pero al menos hay que intentar que cuando se aborde ese debate se haga con el máximo consenso posible y si se quiere buscar un modelo de estado en el que la mayoría de los ciudadanos y los entes territoriales que lo integran se puedan sentir mínimamente cómodos lo primero es tener la voluntad de compartir un proyecto de convivencia que hasta ahora ha sido exitoso

sobre propuestas concretas no en el aire porque las reformas de los edificios se hacen con un proyecto constructivo que concreta los puntos en los que se va a actuar

no en base a declaraciones eso es lo que nosotros planteamos en la enmienda a la totalidad que hemos presentado

en un cruce de enmiendas declaraciones y posturas no sé si se aprobará ninguna porque no me parece que sea muy operativo este procedimiento

discreta de forma tranquila con ánimo constructivo de llegar a acuerdos entendiendo que es un problema difícil en el que hay que tratar de cuajar todos los consensos

en este sentido un planteamiento que nosotros pensamos que es sensato constructivo y que busca integrar posturas y aspiraciones diferentes en un marco compartido

podrán pensar otra cosa pero pensamos que es un mínimo común denominador que puede servir a los nacionalistas que puede servir a los señores del pp y upyd y desde luego a nosotros nos parece que en este momento es el que nos permite

pero la búsqueda de ese modelo es evidente que requiere una reforma de la constitución y sobre cuál ha de ser la orientación y la intensidad de esos cambios pues seguramente habrá distintas opiniones pero creo que lo que nadie cuestiona es que la revisión de la constitución se debe hacer siguiendo los procedimientos legales establecidos y nosotros hemos intentado hacer los deberes y los traemos

hemos hecho un diagnostico hemos reflexionado sobre los cambios que entendemos que necesita la constitución después de casi treinta y siete años y hemos hecho una propuesta para su reforma un diagnóstico y una propuesta que desde luego no son cerradas no pueden serlo si se trata de que sea una propuesta compartida son propuestas abiertas que estamos por supuesto dispuestos a discutir para incorporar a otras opiniones y a otras sensibilidades

es qué modelo de estado queremos qué reformas creemos que hay que abordar y cómo hay que acometerlas no sé si el resto de partidos políticos lo tiene así de claro es lo que hicimos en junio en julio de dos mil trece en el llamado documento de granada

al proponer un nuevo pacto ciudadano para la reforma constitucional la regeneración democrática y el fortalecimiento de derechos y libertades un pacto

el primero blindar el sistema de derechos libertades y la igualdad de todos los ciudadanos fijar constitucionalmente en qué consiste nuestro estado social educación pensiones igualdad para que nadie se pueda permitir el lujo de rebajarlo con la excusa de la crisis o del déficit público en segundo lugar modernizar nuestra democracia ampliando los espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones asegurando la transparencia en el funcionamiento en las instituciones públicas y los partidos políticos

y tercero transformar la españa autonómica en la españa federal resolviendo las muchas disfunciones que el estado de las autonomías ha venido teniendo de estas tres décadas largas de experiencia tiene una reforma que delimite con nitidez la atribución de competencias entre la administración central y las

la inmensa mayoría de los conflictos de competencias en el tribunal constitucional por qué porque no estaban claras que establezca también instrumentos concretos de cooperación

que reconozca de forma eficaz y de verdad las singularidades y los hechos diferenciales de algunas comunidades autónomas como la nuestra garantizando al mismo tiempo

a ese primer punto que decíamos del acceso a los servicios públicos básicos ese es en líneas generales el modelo que planteamos los socialistas en el conjunto de españa y aquí también

porque creemos que es el que a nuestro entender puede conciliar en un marco común de convivencia dentro de una europa que queremos que sea de progreso el respeto a la pluralidad de sentimientos

y lo concilie con el disfrute en igualdad de los derechos básicos de ciudadanía consideramos que este es el esquema no pensamos que pueda ser el único es el nuestro es el que nosotros hemos trabajado es el que creemos que conviene al país pero por supuesto

de discutirlo y de abrirnos a otras posibilidades y a otras opciones porque esto no va a ser flor de un día hoy probablemente hagamos este ejercicio de literatura o de retórica como usted quiera y nos vayamos todos muy satisfechos habiendo contado cada uno nuestro libro

ni es el procedimiento para hacerlo esto se hace de otra manera con acuerdos amplios entre partidos y eso hay que hacerlo de forma discreta y desde luego no con el ánimo de imponer nadie su postura pero sí claro y el que todos tengamos la convicción de que vamos a intentar al menos que se pueda lograr un acuerdo esa es nuestra forma de abordarlo y aquí en euskadi entiendo que también debiéramos abordar el debate sobre la actualización de nuestro autogobierno del autogobierno vasco una actualización que no solo hay que plantear

sino también hacia adentro respecto al marco de relación de euskadi con el estado por supuesto pero también y con más urgencia y entiendo que más fácilmente porque no tenemos que recurrir a nadie más es nuestra competencia internamente aquí en euskadi porque nuestro país españa tiene problemas euskadi también los tiene y este país está pidiendo a gritos una revisión del entramado institucional

tenga servicios públicos y de calidad y que sean los mismos para todos independientemente del territorio en el que cada uno resida

mucho más sencilla de acometer la otra afecta al conjunto del estado no hay

con el resto de españa pero esto nos compete a nosotros en exclusiva no dependemos de nadie más tenemos todas las capacidades solo nos hace falta la voluntad política para abordarlo de verdad para que lo que se acuerde repercuta en la vida diaria de la gente en su mejora esa es

hacia fuera y hacia dentro que los socialistas vascos estamos absolutamente dispuestos a discutir

a veces da la sensación de que hay quien confunde lo que el reglamento de la cámara permite con lo que el reglamento de la cámara impone es decir el reglamento permite que una interpelación de un partido de un grupo parlamentario al gobierno

es muy diferente señor maneiro porque a veces parece que usted lo confunde es muy legítimo muy razonable y es

lo que permítame que le diga con todo el respeto es que no nos parece políticamente razonable

por otro tipo de intereses y que tengamos que venir aquí a debatir sobre cuestiones sobre la que ya hemos hablado sobre la que usted sabe cuando presenta esta moción que no va a llevar a ningún sitio

contra un muro porque sino cómo se entiende

que alguien pueda plantear que usted pueda plantear en esta cámara no ya como hipótesis sino como algo rotundo y cerrado la aceptación de promover un estado federal simétrico y solidario es decir que este parlamento exija pida al congreso de los diputados algo muy concreto no da lugar a debate tiene que ser esto

y después dígame cualquier decisión sobre el modelo territorial del estado y ahora se lo voy a desarrollar un poco más esta primera tesis se haga a través de los procedimientos legales establecidos obviamente pero es que la política además señor maniero y esto es algo que su grupo

además de seguir el procedimiento legal establecido para cualquier tipo de reforma y más obviamente una constitucional pero la política además exige que para ese tipo de reformas tenga generosidad haya consenso haya altura haya sentido de estado

señor maneiro porque hay determinadas materias que sin generosidad sin altura sin sentido de estado y sin humildad es imposible de abordar

la constitución no nació desde la imposición nació desde el consenso consenso que permitió precisamente que la constitución fuera una realidad desde la generosidad en la que unos y otros se fueron dejando cosas en el camino para buscar ese consenso que hizo posible la constitución

solo desde la generosidad solo desde la altura de miras que quienes redactaron la constitución tuvieron podrá ser hipotéticamente reformada o se podrá abordar una hipotética reforma no desde planteamientos como este cerrados

como un altavoz propagandístico legítimo pero

quienes en aquel momento tuvieron la inmensa responsabilidad de redactar una constitución de acordar un texto constitucional en un momento especialmente sensible para españa

los partidos representados en las cortes constituyentes hoy lo que usted plantea sabe perfectamente que no va a ser aceptado que es imposible que sea aceptado por todos y menos de una manera como la que usted la ha planteado si es que incluso tuviéramos alguna capacidad

y es que huyeron de la imposición de las mayorías sobre las minorías la pregunta que cabe hacerse hoy hay capacidad viendo esa actitud además la que usted hoy ha reflejado

existe hoy esa generosidad esa altura y se dan las condiciones y las circunstancias para que haya altura de miras para que haya generosidad para que haya humildad yo sinceramente y lo lamento mucho lo dudo

y claro antes de enfocar ya la finalización de mi intervención yo quiero hacer un repaso también

siempre se le olvida la constitución trajo estabilidad política trajo estabilidad política trajo progreso

y trajo el mayor impulso económico y social posible desde luego el mayor impulso económico y social que ha experimentado en la historia moderna este país y a veces cuando oigo algunas reflexiones sobre qué debemos de ser qué debemos dejar de ser

en boca de algunos echo en falta ese poner en valor ese recordar prestigiar

que le he dicho es verdad que el mundo evoluciona que el mundo se transforma la sociedad cambia españa se transforma euskadi también

de las que nos dotamos para convivir pues tienen que adaptarse también a esa evolución a la lógica evolución de las cosas es verdad que

y desde luego también la constitución tiene que seguir evolucionando con la propia evolución de la sociedad

pero yo creo que tan importante como acertar en el qué hay que modernizar qué hay que cambiar es cuándo y cómo y en ese cuándo y en ese cómo sin duda alguna

presididos sobre todo el cómo por esa generosidad

por esa altura de miras y esa ausencia de partidismo que en ocasiones es demasiado evidente muchas gracias eskerrik asko sémper jauna